muchas gracias presidenta buenas tardes a todos y a todas buenas tardes señor lehendakari

vuelvo a traer a la consideración de la cámara un asunto que hemos traído en varias ocasiones durante los últimos años

clásica una reivindicación histórica de unión progreso y democracia que en los últimos tiempos algunos otros grupos están apoyando por necesaria creo sinceramente

este plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal antes o después se va a poner en marcha en euskadi creo sinceramente que esto va a ser así a pesar de las dificultades que han venido poniendo en los últimos tiempos especialmente los partidos foralistas creo que la realidad ante la cual nos encontramos

foralistas van a modificarse como por cierto en su enmienda transaccional en la que han firmado el partido popular

introduce alguna novedad que años atrás

vemos que los partidos que han venido defendiendo una posición contraria a que se ponga en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal

lo que nosotros queremos poner encima de la mesa y es que con voluntad política

se puede hacer algo más o mucho más para luchar entre todos contra esa lacra que es el fraude fiscal siempre pero especialmente en momentos como la actual momentos de crisis económica momentos

presupuestarias por lo tanto creo que

vamos a conseguirlo porque euskadi lo necesita y porque los ciudadanos vascos lo necesitan y porque estos presupuestos lo necesitan y porque los próximos presupuestos que vengan en años siguientes lo necesitan también por lo tanto

en los últimos tiempos aunque ciertamente siguen sin estar cuantificados

y esos logros en materia de lucha contra el fraude fiscal pensamos que puede y debe hacerse más especialmente pensamos que es indispensable cerrar la puerta

a los defraudadores y poner en marcha por lo tanto lo que

para como digo cerrar todas las puertas a los defraudadores efectivamente nosotros habíamos planteado una iniciativa original que venía a defender la puesta en marcha por parte del gobierno vascos de este plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal ahí en la iniciativa están

medidas que debería desarrollar este plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal la mayoría de las cuales o todas ellas han sido finalmente trasladadas a la enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo socialista y

el primero de ellos es algo que nosotros consideramos que también es importante

y para en definitiva pueda explicar qué es lo que este plan ha dado de sí y qué objetivos ha cumplido para proceder a las mejoras pertinentes en caso de que los resultados no fueran satisfactorios y por lo tanto poner en marcha una actualización permanente una mejora permanente

la situación de crisis económica en la que nos encontramos nos obliga a replantearnos y analizar la política fiscal de modo que podamos habilitar e impulsar la política fiscal

y que mejores resultados obtenga para el conjunto de la sociedad que sirva para impulsar la actividad económica y para mantener el estado

los representantes políticos estamos obligados a impulsar todas las medidas que sean necesarias para ir reduciendo progresivamente el fraude fiscal y la elusión fiscal

y rompen la igualdad ciudadana el fraude fiscal es un problema existente no solo en euskadi y en españa sino en el conjunto de la unión europea hay muchos pasos pendientes de dar de hecho desde el dos mil cinco la comisión europea a puesto en marcha un buen número de comunicaciones

para combatir el fraude siempre con la aclaración de que la responsabilidad depende en última instancia de cada estado miembro más allá

de españa medidas por lo demás claramente insuficientes y muy mejorables en nuestra opinión desde euskadi

y ampliar las actuaciones públicas contra el fraude en muchos casos solo depende

de los representantes de los ciudadanos ponerlas en marcha desde luego las estrecheces económicas y presupuestarias nos obligan a ello nos obligan a redoblar nuestras fuerzas

el fraude fiscal perjudica la financiación de la administración fomenta la insolidaridad y la injusticia y distorsiona la actividad económica el fraude fiscal reduce el estado del bienestar y el gasto social el fraude fiscal

a pesar de que las competencias en política fiscal y lucha contra el fraude corresponden a las diputaciones forales

del gobierno vasco un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal tal como en su momento por cierto recomendó el propio consejo asesor para asuntos económicos al anterior lehendakari como decía hemos firmado una enmienda transaccional con el grupo socialista que esperamos que pueda salir a delante en este pleno ahí se recoge todas estas medidas que en nuestra opinión deberían ser necesarias que debería recopilar este plan de lucha conjunto contra el fraude fiscal añadimos la necesidad de que el gobierno

la evolución del plan y los resultados obtenidos y en último lugar como tercer punto volvemos a reiterar nuestro rechazo a la amnistía fiscal aplicada por el gobierno de españa creo sinceramente que nadie debería oponerse a esta iniciativa no veo que problema puede tener ningún grupo para apoyar esta iniciativa

de las diputaciones forales a los intereses de los ciudadanos y creo que nadie debería refugiarse en las competencias de las diputaciones forales para no impulsar todo aquello que sea necesario para luchar contra el fraude fiscal creo que este es el asunto de la cuestión creo que nadie debería refugiarse en el hecho de que las competencias estén en manos de las diputaciones para no poder hacer algo más en la lucha contra el fraude fiscal en definitiva ahí está nuestra transaccional agradezco al señor prieto la firma de esta transaccional gracias

muchas gracias señora presidenta señor maneiro muchas gracias por traernos un tema novedoso una vez más a este parlamento

no sé para qué hacemos plenos monográficos y discográficos como decía otro parlamentario hace solo

sobre este mismo tema le voy a leer lo que usted decía a una iniciativa del señor mikel arana hace escasamente un año y un mes usted decía la verdad es que no tengo demasiado tiempo para intervenir en fin más que hablar genéricamente de un asunto que ya hemos debatido en muchísima ocasiones en este parlamento

que en este asunto concreto que se les planteen medidas concretas para luchar mejor contra el fraude y yo voy a posicionarme sobre cada una de ellas

porque se le ha olvidado su discurso de hace un año le voy a decir sobre lo que usted propone impulso de formación continua de los inspectores fiscales

existe reforzamiento y agilización de los mecanismos de colaboración coordinación transparencia intercambio existe se hace se mejora cada vez más

elaboración de un plan de prevención y detección de bolsas de fraude tal lo tienen todas las administraciones tributarias

no sé si usted no se ha enterado se han modificado se han modificado

cuando habla de las sps sí se han modificado no sé si no se ha enterado es decir ya está hecho sus medidas concretas yo no

aumento de sanciones tributarias y de los plazos de prescripción no sé si lo sabe también está hecho por cierto

sin su voto sin el voto de upyd allí donde podía votar que era en el congreso de los diputados

a incrementar las penas por delito fiscal o sea a pesar de ustedes se ha hecho realización de campañas que promueven la responsabilidad ciudadana

quedar por quedar para darse abrazos está muy bien pero para eso estamos nosotros en este parlamento

de abracitos y a partir de aquí qué quiere usted que le diga pues mire usted le hemos presentado exactamente sí la misma enmienda que llevamos presentando desde hace cuatro años

las diputaciones no luchan contra el fraude fiscal el

casi mejor que sigan donde están y en cualquier caso si le parece nosotros estamos dispuestos a celebrar otro pleno monográfico sobre fiscalidad

amnistías fiscales si usted quiere esa que usted critica tanto porque según usted es una amnistía pagar el diez por ciento pero supongo que según los grupos de esta cámara y los que mantienen y apoyan la legislación fiscal por ejemplo en gipuzkoa

para lo mismo que es la legislación que tenemos hoy vigente no sé yo usted cómo lo calificará eso

como ustedes lo quieran llamar fiscal sobre el fraude pero con una condición hasta el año que viene no vuelvan a meter lo mismo en este parlamento y podremos hablar de cosas más interesantes y más útiles porque también le aseguro una cosa aunque votáramos lo que usted ha planteado

la recaudación seguiría siendo la misma su propuesta para combatir el fraude fiscal es cero eskerrik asko damborenea jauna

ez gaudelako ados plan bat egitearekin no estamos de acuerdo con la elaboración de un único plan lo hemos comentado con todos los grupos

las competencias de cada una últimamente también es cierto que escuchamos a muchos grupos

salvaguarde el autogobierno de las injerencias que desde madrid se realizan sin embargo

no tienen ningún pudor en saltarse las competencias desde este parlamento hacia otros territorios

y que entendíamos el mismo como un proceso de mejora continua en donde ir mejorando y perfeccionando

a cada vez más agentes que pudieran facilitar el objetivo final de una fiscalidad más justa en todo este proceso también hay que tener claro que desde

las competencias de lucha contra el fraude fiscal es en los territorios históricos y seguimos considerando

es el que debe regir en este caso también debemos promover unas administraciones más cercanas a los ciudadanos

están no solo elaborando nuevos planes y mejorando los anteriores sino que los están compartiendo entre ellos que están obteniendo mejores resultados y según los datos que he podido recopilar desde el año dos mil ocho han realizado más de un millón ochocientos mil actuaciones en la cav

que vienen son recurrentes temas como la interconexión de bases de datos

son recurrentes y son temas como el anterior debatiente

damborenea ha expresado se están realizando ya en muchas de las justificaciones que hemos podido oír o leer

fiscal se dan distintas cifras hemos oído últimamente

hemos podido leer en la justificación del portavoz de upyd que españa es el décimo país contra el fraude fiscal

indagamos más en esos informes y vamos a fuentes diversas nos encontramos que tampoco es la décima

en la página web de justicia the tax justice donde viene ese dato también se habla de que españa es la treinta

pues no es cierto que estemos a la cola del mundo sino que está más centrada en el

que nos encontramos pero además de que no sea cierto que

en españa sea el décimo en el mundo queremos traer otro informe a colación hoy que es el que acaba de realizar

de la comisión europea que ha promovido un informe que mide la calidad de los gobiernos y su variación regional y subregional elaborado por el instituto de ciencia política

donde se analiza la calidad de la gobernanza donde se miden todas estas cuestiones y como no podía ser de otra forma se mide la calidad de las haciendas

de que un gobierno democrático no es suficiente su calidad además pasa por una adecuada solución de cuatro elementos adicionales que es tener buenas leyes y aplicarlas bien

controlar y erradicar todas las fuentes de corrupción la calidad y eficiencia de las burocracias y del funcionariado o la fortaleza y la calidad

y este análisis que digo presentar la comisión europea se analizan ciento setenta y dos regiones europeas de dieciocho países

que existe una notable diferencia entre la calidad de las instituciones

y resulta que la comunidad autónoma vasca ocupa el primer puesto dentro del estado español que es la veinticinco de ciento setenta y dos entre las regiones europeas los propios investigadores estaban tan sorprendidos de los resultados

sus estudios que realizaron un estudio específico explicando cuál era el caso vasco y

institucional vasco que hacía que la calidad de sus instituciones incluida las haciendas forales estuviese por encima de la media europea entre las mejores europeas y por supuesto como la mejor del estado añadía entre los factores a analizar

de organizaciones sociales no atadas al favor o beneficio de poderes políticos hablaba

en una cohesionada diversidad comprometidos con la sociedad de las que son partícipes

hablaba de que se facilitaban los sistemas de comunicación de transparencia de denuncia activa en las decisiones y malas prácticas o comportamientos hablaba de la

de la asunción del riesgo propio cosa que los que queremos conocer el concierto económico compartimos la asunción de riesgo propio tanto fiscal como financiero

es obviamente solo un informe como cualquier otro que hemos podido recibir aquí pero creo que nos coloca también en una mejor perspectiva sobre lo que estamos analizando y del mismo modo que cuando analizamos las cajas

quiero decir que no todas las instituciones no todas las haciendas actúan igual por lo tanto no todas las recetas tienen que seguir siendo las mismas

en sus fortalezas en aquello que ha hecho que sus instituciones sus gobiernos hayan obtenido estas calificaciones así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo

nuestro tejido propio tanto lo institucional como los modelos de gobernanza o los modelos socioeconómicos eskerrik asko eskerrik asko

presidenta señorías el señor maneiro nos propone

que se haga de forma conjunta para los tres territorios contemplando como mínimo una serie de medidas que son las que establece en su iniciativa y que después han sido ampliadas con la enmienda transaccional efectivamente hemos hecho hace muy poco tiempo un pleno de fiscalidad en ese pleno de fiscalidad se han contemplado muchas medidas en la lucha contra el fraude fiscal exactamente diecisiete de setenta y uno que fueron aprobadas

está presentada antes de que se hiciera ese pleno de fiscalidad que

reiteración no en el aspecto central de esta iniciativa que es que haya un plan de lucha contra el fraude fiscal en el conjunto del país vasco

muchos planes sino que haya uno y que ese plan conjunto tenga

las mejores herramientas para ser eficaz en la lucha contra el fraude fiscal

es cierto como dice el señor damborenea que hay una cierta reiteración en estos debates como es igualmente cierto que hay una reiteración

la pregunta que nos tendríamos que hacer es si a pesar de los reiterados debates si a pesar

si a pesar de las reiteradas herramientas sobre las que hablamos hay más menos o el mismo fraude fiscal

con las proporciones razonables de ciclos económicos un tanto diferentes y el problema es que estamos ante una lacra

se calcula en aproximadamente dos mil quinientos millónes de euros

se dejan de ingresar en la economía vasca como consecuencia de la economía sumergida y del fraude fiscal que está relacionado con esa economía sumergida por eso los debates podrán reiterarse podremos tener la sensación de reiteración pero tenemos también un compromiso y una obligación como representantes políticos de perseguir el fraude fiscal de hacerlo

porque en realidad hay mucho dinero que está en manos de quien no debe que se oculta al interés público al interés general y que necesitamos llegar hasta esos recursos

y para que todo el mundo tenga las mismas obligaciones no solamente los mismos derechos para que la contribución a lo público sea por todas las partes

cansarnos debatiendo será mejor que nos cansemos debatiendo siempre buscando ese interés general de ir atajando el fraude fiscal que el darlo todo por hecho o por sabido y que sin embargo como daré luego algún dato

de lucha contra el fraude fiscal donde a pesar de las cosas que se hacen que claro que se hacen y claro que hay que ponerlas en valor todavía el montante de fraude fiscal es extremadamente importante en estos días hemos tenido alguna noticia precisamente en la lucha contra el fraude fiscal que a nosotros por lo menos nos crea una cierta inquietud nos crea alarma y también quizás alguna perplejidad porque son noticias realmente confusas sobre qué está haciéndose y qué está saliendo qué está en esa lucha contra el fraude fiscal en estos días hemos asistido a una noticia en que las diputaciones según los datos que ellos ofrecían decían lo siguiente la diputación foral de bizkaia

en el año dos mil doce cuatrocientos cincuenta y cuatro coma dos millónes de fraude en la tributación esto significa según este dato

menos que el año anterior a pesar de los múltiples y los reiterados debates a pesar de las múltiples y reiteradas herramientas que desde la política parece que se plantean

pero este es un dato que está publicado que nadie lo ha contestado y que nos produce como decía una cierta alarma y una cierta perplejidad también en esa noticia se decía

y que la de álava lo hizo en ciento treinta y uno millónes en total novecientos ochenta y siete millónes de euros si esta cantidad o un setenta por ciento de ella

se hubiera recaudado efectivamente las instituciones vascas en estos momentos no tendrían que hacer los severos recortes que están aplicando en sus presupuestos

imponibles defraudadas a las que habría que aplicar luego el tipo correspondiente del impuesto para calcular lo realmente recaudado el balance de la actuación contra el fraude fiscal

escaso porque como también se ha dicho y además se ha estudiado al respecto el peso de la economía sumergida en el país vasco

del producto interior bruto por lo tanto estos datos han motivado que

aunque alguien pueda sentirse cansado por tener que trabajar en la lucha contra el fraude fiscal han motivado que el partido socialista haya pedido

que los tres diputados de hacienda de las tres diputaciones forales

en la comisión correspondiente y nos den una explicación más detallada más exhaustiva de esta lucha contra el fraude fiscal y de los resultados que se están ofreciendo porque además si realmente hay resultados y los resultados pudieran calificarse de una mejor manera esto daría cierto a esta lucha contra el fraude fiscal que a veces es difícil sorda dura y que necesita del estímulo de que se van consiguiendo cosas porque también tiene un carácter persuasivo el que así se pueda apreciar por lo tanto nosotros hemos querido

trabajar en favor de esta iniciativa porque si lo que abunda no daña pues siempre será bueno y esto por abundar no daña

con ideas con propuestas que también nosotros las hicimos antes del pleno de fiscalidad que por eso también tienen una cierta reiteración pero que tienen sobre todo y es la virtud como dice la propia iniciativa del señor maneiro de estar permanentemente a la carga de estar permanentemente revisando este asunto y de motivar para que la lucha contra el fraude fiscal no decaiga sino que tenga siempre detrás de el impulso de la política en este caso el impulso de esta cámara porque es para beneficio del conjunto de la ciudadanía vasca y por eso por encima de la reiteración hay nobleza en esta propuesta y nosotros

a ese trapo sí entramos lo hemos hecho hemos hecho una enmienda

y esperamos lo mismo que ha citado el señor maneiro que esta enmienda transaccional pueda contar con la mayoría de esta cámara y si es así

de un plan para el país vasco donde estén todos de lucha contra el fraude fiscal y probablemente estaremos dando un paso más un paso más de importancia para que el fraude fiscal se vaya reduciendo y para que los ingresos públicos se vayan aumentando y para que todo el mundo que contribuye con sus impuestos sienta

concernido en ella y que por lo tanto también desde esa perspectiva no se plantee ese criterio o esa política de desigualdad que existe entre quienes no tienen obligaciones y quienes sí tienen obligaciones y como nosotros creemos que la sociedad solamente se puede constituir dignamente solamente puede funcionar dignamente con derechos y deberes en planos de igualdad y en planos de justicia social

para conseguir esa igualdad y esa justicia social y por eso estamos apuntalando esta iniciativa y nos sumamos con esa enmienda transaccional usted puede hacer también lo mismo y le aseguro que se va a sentir mucho mejor

en la lucha contra el fraude fiscal eskerrik asko

quince el fraude vuelve a ser un tema recurrente una vez más euskal herria bilduk

sin duda ahora hablamos en términos diferentes ya que por lo que parece para algunos de los grupos el problema actual gira en torno al papel de las diputaciones

el fraude fiscal y el papel que debe tener o tomar el gobierno vasco ante el cual y no es casualidad que durante la semana pasada algunos de los portavoces de los partidos políticos aquí representados y que han vuelto a repetir lo mismo

de una cierta dejadez a la hora de hacer aflorar el fraude e iban más lejos al hablar de falta de transparencia en los datos aportados por las mismas

ya que por lo que parece no se sabe muy bien si lo que pretenden es mejorar el modelo actual o por lo contrario intentar modificar por la puerta de atrás el sistema vasco de fiscalidad

modificando a los actores de dicha recaudación fiscal la lucha contra el fraude debe ser asumida como una de las claves para la pervivencia de lo público el problema que aparece aquí es que por lo que parece es ahora para algunos cuando han descubierto que el fraude fiscal es un escollo importante

de una política ciertamente permisiva es decir parece que algunos han visto la luz y reconocen ahora todas las debilidades existentes

fraudulentas en relación a la fiscalidad y no solo eso sino que encima señalan a los culpables dentro de las administraciones y les acusan de cierta falta de transparencia

que también deberíamos reflexionar todos en esta cámara sobre qué razones nos han traído hasta aquí porque la economía sumergida como ya se ha dicho y se ha reconocido anteriormente

en la actual situación de crisis económica parece que ese porcentaje incluso podría llegar a ser mayor pero volvemos a situar el problema en el conjunto de la ciudadanía una vez más incluso a la hora de hablar de creación de un sistema informático para el control del fraude a lo que se acaba aludiendo es a las prestaciones sociales y a lanbide

pero tristemente creo que fue aprobada entre los setenta y uno puntos

el new york times hace ya un tiempo escribía sobre el fraude fiscal del estado español y decía esto esta práctica es muy común entre las grandes familias

el fraude fiscal en estos sectores es enorme según la propia agencia tributaria española el setenta y cuatro por ciento del fraude fiscal se centra en estos grupos con un total de cuarenta y cuatro mil millónes de euros que el estado español incluido el central y los autonómicos

esta cantidad por cierto casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social del estado español

es decir el gasto que el estado español debería gastarse en su estado del bienestar sanidad educación escuelas de infancia servicios a personas con dependencia y otros por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el estado no recoge tales fondos y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados vuelvo a recordar grandes familias grandes empresas y la gran banca la consecuencia de su influencia

dentro del estado es lo que provoca que este no se atreva a fiscalizarlos

la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la agencia tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales y sociedad en general cuyo fraude fiscal al menos el de los autónomos y profesionales liberales según los técnicos de la agencia tributaria del estado español solo es el ocho por ciento del fraude total y es que

y volvemos a centrar nuestra mirada en ese ocho por ciento que no está mal pero parece insuficiente si no concretamos medidas para el otro setenta y cuatro por ciento recordemos que en la comunidad autónoma del país vasco también hay las llamadas grandes familias con sus grandes fortunas también quedan

mientras que se van cerrando las demás y por supuesto que también hay gran banca sin olvidarnos de la iglesia en definitiva es la organización que más defrauda ya que no paga impuestos y encima consigue financiación adicional a través

a los defraudadores ya les hemos puesto nombre vayamos a por ellos

situémoslos como los grandes estafadores del estado de bienestar hagamos una campaña de concienciación

que por culpa de lo que han robado o no han declarado estos cuatro grupos hoy la sanidad la educación los servicios a la dependencia etcétera

hagamos público que ellos son los culpables parece que desde los poderes políticos e institucionales durante toda la vida lo que se ha hecho ha sido mirar para otro lado regalarles amnistías fiscales y cargar con mayor presión fiscal al conjunto de la ciudadanía y todo para que unos paguen lo que otros no hacen hay voluntad de hacer esto

al menos si no se concretan medidas activas ya mismo orain aldundiak lanera jarri dira iruzur fiskala kobazulotik ateratzeko

para concluir diré que el fraude es posiblemente la mayor estafa social que existe el mayor cáncer de cualquier sociedad que pretenda mantener y consolidar un sistema público que garantice la vida digna de las personas y el acceso público a los servicios el fraude y los defraudadores son en definitiva nuestro enemigo a abatir pero me gustaría volver a recordar una cosa

y que se dedican a intentar huir de sus responsabilidades fiscales la gran masa del fraude como ya lo he dicho antes

la banca y la iglesia y eso es más de un setenta por ciento de lo que se llama fraude fiscal vayamos a por ellos entonces

seamos justos y no tiranos con la ciudadanía demostrémosles que al menos en esta institución somos representantes de la ciudadanía y no de los poderes económicos del país

en definitiva que queremos acabar con el cáncer del fraude fiscal de una vez en mi siguiente intervención pasaré a hablar de cuáles han sido los acuerdos

sí gracias presidenta efectivamente puede que tenga razón el señor damborenea en que me reitero en lo que básicamente vengo proponiendo en este

me reitero pero es que lo cierto es que usted también se reitera de hecho usted viene diciéndome

no hace falta nada de lo que usted propone y no hace falta porque ya se está haciendo digamos que esto es lo que usted ha venido diciendo

es decir no ha habido ningún tipo de mejora en la lucha contra el fraude durante los últimos cuatro años es esto lo que usted está diciendo

en los últimos cuatro años porque si ha habido algún tipo de mejora quiere decir que teníamos razón los que decíamos hace cuatro años más y mejor contra el fraude fiscal que por cierto es lo que ha venido diciendo el partido nacionalista vasco en los últimos cuatro años en esta cámara básicamente lo mismo se nos decía no es para tanto la situación no es tan grave ya se está haciendo mucho

no estamos de acuerdo en esto y por qué se han venido produciendo estos cambios

que nosotros incorporamos en la transaccional ya se está haciendo en los últimos tiempos o ya se ha puesto en marcha por qué me imagino que habrá sido porque habrá diferentes grupos en esta cámara o en las juntas generales que han puesto este asunto encima de la mesa y efectivamente a base de reiterarse y a base de

algunos cambios han venido produciendo y desde luego porque la situación económica es tan grave que aquellos parlamentarios y aquellas fuerzas políticas

excesivas ganas de trabajar en los últimos años se han puesto las pilas y han asumido que este es un gran problema que existe

que tiene euskadi y el fraude fiscal a día de hoy es uno de ellos y efectivamente mucho se puede hacer obviamente

eesta iniciativa la defendimos durante la pasada legislatura en diversas ocasiones al haber un cambio de gobierno lo que hacemos es proponer a este nuevo gobierno haga lo que pensamos es necesario hacer y en concreto poner en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal lo cierto es que el grupo

que lo que se hace no es suficiente e incluso insta o pretendía instar con esa transaccional al gobierno vasco a hacer algo que hasta ahora no ha hecho

hay un cierto avance en la postura del grupo nacionalistas vascos para plantear a una iniciativa concreta en concreto esta de la que ustedes hablan ustedes proponen la creación de una comisión de lucha contra el fraude es necesaria esta comisión o ya se está haciendo suficiente contra el fraude el gobierno vasco va a plantear la puesta en marcha de esa comisión

o la introducción de esa comisión era simplemente un intento de última hora para tratar de convencernos al grupo socialistas vascos

esta enmienda de transacción era un juego político o sinceramente ustedes piensan que la puesta en marcha de esta comisión de lucha contra el fraude

es necesaria se me explique y efectivamente hay muchas cosas que se están haciendo

termino el señor damborenea venía a decir que esto ya se hace y tal bueno

no se hace el impulso de la formación continua de los inspectores fiscales no se hace a día de hoy

la interconexión informática en tiempo real de las bases de datos tributarias no se hace a día de hoy el reforzamiento y agilización de los mecanismos de colaboración que proponemos si se hace debe hacerse más y mejor la promoción de convenios con colectivos profesionales y empresarios no se hace

cómo van los planes de lucha contra el fraude fiscal tampoco se hace y por lo tanto son medidas nuevas y concretas que nosotros proponemos que esperamos en los próximos meses a base de insistir y de que uno se reitere puedan

hacerse realidad por lo tanto insistiremos en este asunto mientras exista fraude fiscal en euskadi nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

señor maneiro desde hace cinco años

eso es lo que dicen nuestras enmiendas desde hace cinco años y desde hace cinco años les instamos a las diputaciones forales

dice usted en los últimos tiempos ha habido cambios responderá a las iniciativas de upyd

pues no señor maneiro no sabe a qué responde a que hace un año hubo un cambio en el gobierno de españa

y propuso una serie de medidas de lucha contra el fraude fiscal que ustedes no apoyaron

no apoyaron y que en un año ha conseguido recaudar un diecisiete por ciento más de lucha contra el fraude fiscal que el ejercicio anterior

y qué ha ocurrido en el país vasco que se han trasladado esas medidas a las normas forales como no podía ser de otra forma salvo el endurecimiento de las penas para los delincuentes fiscales

eso es lo que ha cambiado señor maneiro eso es lo que ha cambiado eso es lo que ha cambiado nada más

permítame que le diga usted no sé por qué viene a hacer este debate que tampoco lo hacía antes

y es incongruente porque su planteamiento es que aquí no tengamos ninguna competencia fiscal su planteamiento

actividad de inspección fiscal sea de la agencia tributaria ese es el planteamiento de su partido entonces no entiendo a qué viene usted a ponerse aquí una medalla autonomista en esta materia cuando su planteamiento es la desaparición del concierto económico y de cualquier competencia fiscal

este travestismo de cuatro años en esta materia por su parte

solo les voy a decir una cosa dejen de buscar culpables en el mundo mundial en la gran banca internacional en todas esas cosas siempre la culpa de todo la tiene todo el mundo yo solo se que hoy

o la mitad de la mitad de ellos en un paraíso fiscal y quisiera regularizar mi situación fiscal yo me empadronaría en gipuzkoa y sabe cuánto pagaría

hoy así que por favor no nos vengan a explicarnos a nosotros cómo se defrauda o cómo se elude al fisco lo conocemos perfectamente cómo se está haciendo

y quién lo aprueba y si quieren ustedes mejorar copien íntegramente las medidas de mariano rajoy en el congreso de los diputados

y a lo mejor recaudábamos mucho más y había mucho más dinero para todo ese

y señor prieto me pregunta usted si hay más o menos fraude fiscal yo no sé si hay más o menos fraude fiscal sé que cada vez se recauda más por las inspecciones fiscales por lo menos en españa y eso qué significa que hay más o que se recauda más

en cuantificar en saber dónde está pero que nunca recaudan nada

saben cuántos miles de millónes de euros hay de fraude fiscal saben todos perfectamente quién está defraudando y cuando gobiernan ustedes nunca trincan a nadie

lo cual no deja de ser sorprendente me dice usted

de luchar contra el fraude fiscal no no yo lo que estoy cansado es de hablar y no hacer nada sobre lo mismo desde hace cuatro años

que aquí podemos aprobar los planes que usted quiera y con eso no recaudamos un duro más ahora también le tengo que decir una cosa

según usted aquí hay competencias para hacer ese plan que usted dice que es tan prioritario y necesario me quiere explicar por qué no lo han hecho

si podíamos hacerlo por qué no lo han hecho quiere que le lea lo que decía su portavoz en este parlamento cuando ustedes estaban en el gobierno sobre este tema en una transaccional que aprobaron con estos señores ustedes descartamos la enmienda de upyd porque de forma innecesaria se le pide al gobierno que se invadan competencias sobre cuestiones que no le son propias eso decían ustedes entonces este debate

esta enmienda que no tiene tres años que pactaron ustedes con estos señores cuando ustedes estaban en el gobierno

hoy o antes tenían esas competencias no entendemos cómo la panacea

de todo el fraude fiscal que le hubiéramos solucionado con este plan integral

no lo aprobaron en el consejo de gobierno para que tuviéramos hoy la solución de todos nuestros problemas fiscales y de recaudación

introducido en nuestra enmienda de transacción la creación de una comisión y haber si es creíble o no es creíble etcétera solemos tener la costumbre de cumplir lo que décimos y aquello que afirmamos y nos solemos cuidar mucho de

de una manera firme y porque creemos se lo he dicho creemos en lo que proponemos y creemos en la mejora continua lo he dicho en mi discurso creemos que hay que mejorar

que cuando se refuerza mediante una comisión aquello que se está haciendo aquello que se está haciendo se refuerza mientras que cuando se crea una comisión para hacer algo que no se hace y no tiene sentido lo único que estamos es

entonces preferimos participar en la creación de comisiones

sobre algo que tiene futuro y en la forma de plantear la comisión una comisión técnica entre las agentes que tienen competencias tributarias para que

los resultados de la misma es una cosa que se está haciendo y que mediante una comisión

porque creemos en la mejora continua y porque nos gusta ser cumplidores de nuestra palabra

hoy en día todos los sistemas informáticos de todos los gobiernos del mundo quizás

hoy en día todo está en internet otra cosa es y tan importante como estar interconectado es que se guarde la seguridad de los sistemas

mantienen la ley de protección de datos y que los sistemas de todas las administraciones tienen que cubrir unas seguridades entonces pedir lo que existe

que se salten unas seguridades dígalo tal cual y les diremos que no

abundar no daña abundar en las proposiciones no daña tengo un compañero que suele decir que abundar en el error es contumacia pero yo prefiero decirle que

pero que acordar fortalece y creemos que hemos propuesto una transacción

que aparte de no dañar creo que fortalece nuestro sistema

ningún recorrido entonces es la opción de cada partido

pero si vamos al informe donde salió la cifra dos mil quinientos millónes en un informe

solicitado por el lehendakari el mismo informe decía

las intenciones de llegar a afirmar o a cuantificar el coste del fraude es una teoría destinada al fracaso porque se trata de observar un

y lo máximo que se podría realizar con dichas cifras es construir un indicador imperfecto con los que medir la evolución de dichos cálculos por lo que

no tendría ninguna credibilidad ahora eso es lo que están ustedes planteándonos aquí y

voy a intentar describir

como se suele describir en ciertos ámbitos lo que ustedes hacen esto se describe como demagogia

es una de las treinta y ocho formas que schopenhauer identificaba en el arte de la controversia

demonización lo primero que hay que hacer es buscar una situación un concepto una realidad que todo el mundo detesta

una falsa dicotomía o estás conmigo o estás contra mí eso se le llama

y creemos que nos vale más trabajar para conseguir resultados que esforzarnos en

presidenta solo dos cosas

dos cosas oportunas en el debate que estamos teniendo nosotros no estamos hablando de las competencias

para que este parlamento dé el impulso político que en función de su capacidad tiene para hacer una lucha contra el fraude fiscal

la inspección fiscal está delimitada los inspectores están al servicio de una determinada administración pero este parlamento puede coordinar

políticamente esa lucha conjunta contra el fraude fiscal y por eso aquí se propone que haya un plan pero es que ustedes de alguna forma en su enmienda transaccional es más

van en caminos que no son del todo divergentes

una comisión de las distintas administraciones en la lucha contra el fraude es decir están hablando también de una coordinación nosotros estamos hablando de un impulso estamos hablando de que políticamente este parlamento respalde e impulse le dé valor naturaleza política

tan alejados por lo tanto no haga aquí una disertación sobre

que este es un debate ya demasiado viejo es un debate que ya

que poco a poco lo estamos superando y que efectivamente el parlamento tiene la obligación la obligación ética la obligación política la responsabilidad de hablar de la lucha contra

como cámara de representación del conjunto de la ciudadanía vasca y que a poder ser la lucha contra el fraude fiscal sea una lucha homogénea en el conjunto del país vasco

una desde las competencias otras desde el impulso político ambas complementándose hagamos una eficaz lucha contra el fraude fiscal por lo tanto yo creo que es un debate

asumible y totalmente oportuno en esta cámara y en este momento y decía usted que las izquierdas somos

expertos en cuantificar el fraude fiscal la existencia del fraude fiscal

probablemente tiene usted razón porque es el papel como mucho que podemos jugar en ese planteamiento porque las derechas son expertas en acumular el fraude fiscal

fiscal y si alguna vez las derechas no tienen suficiente con eso

que es hora de poner encima de la mesa medidas concretas y no solo palabras voluntaristas palabras voluntaristas que cuando deben concretarse no se ha hecho ni se hace por parte de algunos grupos la diferencia es objetiva entre unas diputaciones y otras

en dos mil doce un veintiocho por ciento más que en el ejercicio anterior y la cantidad total de fraude detectado en el irpf ha decrecido un catorce más respecto al dos mil once el fraude descubierto en el iva se ha incrementado en un sesenta y ocho por ciento mientras que en el impuesto de sociedades ha subido un veinte por ciento

que el año pasado sumaron una cuantía de seis coma siete millónes de euros

y se debe a que ha cambiado la eficacia y la voluntad tanto por parte de los responsables políticos de la diputación como por parte de los técnicos del departamento de hacienda de gipuzkoa voluntad y recursos decía son dos palabras claves voluntad que se realiza con medidas concretas y medibles

y esa es la política de euskal herria bildu en gipuzkoa y la que aquí defendemos y no la del pasado aquella que creó en base a reglamentos fiscales todo un laberinto de normativas que han permitido la ingeniería fiscal y ahora nos toca a otros

en palabras de ela sindicato muy crítico incluso más con euskal herria bildu

por algo será en definitiva nosotros y nosotras continuaremos la línea de gipuzkoa y no vamos a entrar a apoyar las medidas que lo que piden

y dan aire a la hacienda vizcaína ahogada por los datos de gipuzkoa y contestando al señor damborenea estoy de acuerdo con usted ustedes de fraude saben muchísimo pero de defraudar

si tan fácil es regularizar el fraude en gipuzkoa por qué

empadronado en gipuzkoa en hernani por ejemplo que es por solidaridad con el pueblo español lo ha hecho

si usted tuviese la suerte de tener treinta millónes en un paraíso fiscal usted debería estar en la cárcel si tuviese treinta millónes en un paraíso fiscal eso es donde debería estar

en definitiva a favor de la transaccionada entre el partido socialista de euskadi y upyd ya que se nutre en la esencia de la política de euskal herria bildu
en la diputación de gipuzkoa muchas gracias eskerrik asko

no aquella puerta estaba cerrada y aquella puerta también

por la de servicio han entrado dos personas del grupo nacionalista por la de los ujieres dos personas

y si no revisen las cámaras si no se han apagado

que vuelva a abrir las puertas que toque el timbre y volvemos a votar

la unión europea en su ánimo de potenciar los valores que hacen de los países miembros

tiene una convicción importante en relación a un valor que es profundamente europeo y profundamente arraigado entre nuestra sociedad

el valor de lo sostenible el valor del medio ambiente la unión europea como nuestro grupo en esta cámara cree que aquellas

en verde que piensan y sientan en los valores de la sostenibilidad serán también las primeras ciudades en salir de la crisis lo mismo sucede para las regiones de europa para los estados de europa

aquellos estados que sean más sostenibles que piensen en el medio ambiente como un valor importante serán también ciudades

mejor una sociedad más avanzada la unión europea comparte esos valores de una forma evidente y creo que

un acierto importante que es la ejemplificación de todos esas directivas esas formas de pensar

de sentir el movimiento europeo de lo verde el movimiento de los estados miembros de la unión en relación a lo sostenible con un ejemplo muy gráfico los ejemplos valen más que mil palabras

acierta cuando considera que aquellas ciudades que pueden y deben seguir ejemplos concretos de buenas prácticas para llevar a cabo en sus municipios en sus regiones en sus estados esas políticas de éxito en materia medioambiental

esa iniciativa de la unión europea se vio reflejada en la creación de un premio de un galardón más bien de un reconocimiento

el premio a la ciudad más verde de europa el municipio más verde de europa es más fácil es más práctico

poder compartir iniciativas tomando como referencia aquellos que han acertado o han sabido sumar esfuerzos para alcanzar ese objetivo que como digo es

de los valores medioambientales el sentimiento de los valores ecologistas el sentimiento de los valores verdes bien ese premio es un premio difícil de alcanzar porque analiza variables difíciles también de obtener un resultado

conseguían ese reconocimiento la primera de ellas estocolmo

al norte de alemania copenhague en dinamarca hemos tenido la oportunidad los vascos y su capital vitoria de poder tener ese reconocimiento es la primera vez que este reconocimiento recae en una ciudad aquí es la primera vez que también

y es también una oportunidad para los vascos es una oportunidad para todos nosotros

en materia de sostenibilidad euskadi destaca porque su capital lo hace sino también porque precisamente esa manera de compartir y de sentir que el medio ambiente es un valor que nos debe unir a todos no entiende de siglas

a esa noble causa de hacer de

ciudades donde se pueda hacer más consumiendo menos hacer más y prestar mejores servicios dedicando y consumiendo menos recursos ese premio no es un premio simplemente a los valores ecológicos entendidos así tradicionalmente en el pasado siglo es mucho más que eso para el reconocimiento de esos valores europeos hay que tener efectivamente una buena posición

como las zonas verdes o la calidad del aire o del agua pero también hay que hacer

una especial incidencia en asuntos tan importantes tan ciudadanos como el transporte público sostenible como reciclaje de residuos y también y esto es un acierto de europa la cohesión social no se puede decir que una ciudad o un municipio es verde si no hay cohesión social

los municipios vascos pueden utilizar esa herramienta deben utilizar esa oportunidad como lo hacen otras ciudades de europa para compartir

una sociedad más ecológica una sociedad más sostenible una mejor sociedad una sociedad más comprometida con el medio ambiente traemos esta iniciativa a esta cámara porque consideramos que el gobierno vasco debe seguir

todos los esfuerzos a difundir esos valores los valores que defiende la unión europea que defiende la comisión europea en el ámbito del medio ambiente en todas y cada una de las políticas de los diferentes departamentos unos más que otros que afectan a la vida de nuestros ciudadanos

es un momento también relevante precisamente después de acabar este año de

donde nuestra capital vitoria gasteiz ha ostentado ese reconocimiento el hecho de que con la capital pero con el gobierno vasco con todos los departamentos con todas las instituciones

en ese objetivo de que las iniciativas las inversiones las políticas que se hacen en nuestra comunidad sigan esos mismos criterios que son criterios de éxito y que han impulsado desde hace muchos años muchos responsables públicos que han estado

de diferentes gobiernos en nuestra comunidad autónoma y también aquí en la representación legítima de los ciudadanos en esta cámara en esa iniciativa quiero agradecer la posibilidad de transacción con el grupo socialista y el grupo nacionalista por el enriquecimiento que se ha hecho de una posición

se inicia con este esta valoración que he tratado de resumir en este momento pero que

enriquecido poniendo de relevancia que la unión europea no solamente como bandera de la sostenibilidad los criterios que la comisión europea ha establecido como los más relevantes a la hora de designar o de premiar a los mejores

y premiar a las referencias que deben servir de nuevo de ejemplo para que otros consigan ese objetivo hay más criterios tal y como se ha recogido en la propuesta del grupo nacionalista

también valorar esa posición y entender que hay más principios más estrategias más planes de relieve que suponen y que coinciden una convergencia

más verdes regiones estados más comprometidos con el medio ambiente quiero poner también de manifiesto una posición que creo que es esencial en este en la consecución de vitoria gasteiz nuestra capital

como municipio a la hora de lograr ese objetivo y también precisamente por eso el llamamiento a esta cámara a repetir también si cabe la experiencia a mi modo de ver de éxito sufrida en el ayuntamiento de vitoria

tres claves importantes las que cualquier sociedad una ciudad una región un estado

la primera de ellas es una buena estrategia o un buen plan técnico como sucede en el trabajo que se ha puesto de manifiesto durante muchas décadas en el gobierno vasco en las diputaciones forales y en los ayuntamientos vascos donde el nivel de compromiso es un nivel un nivel importante pero no es la única clave no se puede decir que una ciudad

por la decisión de sus gobernantes solamente hay dos piezas fundamentales

es el respaldo y la complicidad de los ciudadanos y de las asociaciones que también trabajan y a veces de forma beligerante en esta tarea

la complicidad de los ciudadanos es esencial para conseguir que esas políticas se puedan llevar a cabo con éxito y por supuesto esta es la esencia también de traer este acuerdo

y el objetivo que persigue nuestro grupo una de las claves que diferenció a vitoria gasteiz en bruselas respecto a todas las demás candidatas aspirantes al premio de green capital fue y esto es un punto

la unidad política de todos los representantes de la ciudad de vitoria en esa defensa unánime de los valores medioambientales de nuestra capital esa unanimidad política y social que llevó a un escenario poco frecuente de encontrarse

de diferentes partidos políticos todos de la mano todos a una junto con los representantes sociales del movimiento verde tradicionalmente el movimiento verde no es un movimiento que se saque una fotografía con el sistema no es

de las instituciones con el movimiento ecologista normalmente la actitud de reivindicación

no ha sido así en este caso y creo que es una oportunidad para esta cámara también refrendar lo que fue una

para la ciudad de vitoria gasteiz el hecho de que hubiese esa unanimidad entre los grupos políticos nuestro grupo lo ha tratado de facilitar manteniendo

abierta es fundamental que el gobierno vasco traslade ese empuje para que todo lo que tiene que ver con las infraestructuras las políticas y las acciones relacionadas con el medioambiente

tan europeo tan valorado por europa como se recoge en la transaccional que hoy presentamos y que sin duda alguna propugna un horizonte

más sostenibles son también ciudades donde apetece conviene y se vive mejor no es un hecho que se pueda contrastar más que con la experiencia de quienes han dado desde hace muchos años ese paso estamos hablando de un valor como digo profundamente europeo y esto nos diferencia de cualquier otra región

en esto europa está muy a la cabeza euskadi dentro de europa está muy a la cabeza porque también su capital vitoria gasteiz ha estado y está

muy a la cabeza creo también sinceramente que es un momento para que el parlamento vasco pueda significar con esta iniciativa ese reconocimiento a una larga trayectoria donde todos sin excepción los colores políticos han contribuido a ese objetivo que hoy propugna la unión europea y que quiso establecer con un ejemplo bien claro a través de ese galardón que hoy nos ha correspondido y que hemos

jarraitzeko porque en nuestra concepción de pensar en verde no se reduce al bosque heineken señor maroto es diferente nosotros no somos verdes somos

creemos que es totalmente incompatible la percepción mayoritaria hoy en día de buscar el negocio en cualquier ámbito de las relaciones sociales

ya sea en la gestión de los residuos ya sea las finanzas la búsqueda del negocio del rendimiento económico

es incompatible en estos momentos con el mantenimiento la no agresión o el respeto hacia la naturaleza y con el respeto a los derechos

la propuesta del camaleón el camaleón es un reptil que cambia de color para mimetizarse con el entorno creo también que en los últimos tiempos hay muchos camaleones capitalistas que se dan un barniz verde para mimetizarse

en una sensibilidad medioambiental cada vez más extendida en la sociedad pero por ello al igual que el camaleón no pierden su personalidad y siguen siendo camaleones y reptiles capitalistas uste dut

diferentes yo le oigo hablar al señor maeztu y es que no

en ese tipo de sociedad tan capitalista tan movida solo por los mercados por los beneficios económicos por toda una amalgama de maldad que rodea al medioambiente y que encima

somos los protagonistas y los responsables de que todo esto suceda yo también me he leído varias veces la iniciativa del señor maroto y después de escucharle a usted o mientras le escuchaba usted me la he vuelto a leer y es que creo que hemos venido a hablar de cosas absolutamente diferentes

entendía que esta iniciativa era en positivo los valores de la sostenibilidad valores que compartimos

a unas elecciones todos los partidos políticos estamos orgullosos de que vitoria haya sido otorgada el galardón de la green capital así fue en el ayuntamiento de vitoria

la iniciativa que el señor maroto traía aquí que no era más que poner en valor todo lo que hace posible que existan galardones como la green capital

también está involucrada porque es verdad que a todos nos preocupa que

equilibrio entre economía y ecología pero a mí o a mi partido

que lo que no podemos decir es a todo que no no porque en el fondo cuando leemos la enmienda que eh bildu presenta aunque no lo dice de una forma clara dice un no a las grandes infraestructuras un no

llevan trabajando durante tantos años pero yo también he compartido con usted muchos debates sobre medioambiente en esta cámara y el discurso ha cambiado sustancialmente

y unas no voy a decir facilidades porque ha habido muchas veces que se han discutido de muchas cosas pero me parece que

una doble vuelta para encontrar un no sé qué que verdaderamente yo no encuentro

con alguien que no quiere acordar absolutamente nada creo que estos discursos que empezamos a rodear solo hablar de beneficios económicos estos lobbies que introducen en todos los debates sean medioambientales de infraestructuras de sanidad

hablar de es como si hubiéramos creado unos grupos políticos en los que unos son los buenos buenísimos que representan a la izquierda por cierto una izquierda que ustedes a veces van

más antigua de las antiguas me parece a mí y luego estamos los malos malísimos que somos los que

a esta economía de mercado y a este no sé qué como si estuviéramos dispuestos a destrozar cuando hablamos de sanidad la sanidad cuando hablamos de infraestructuras

mire sinceramente leemos la iniciativa del señor maroto

pero a parte de poner en valor los planes programas y directivas europeas a parte de

de la capital verde europea que se le dio a la ciudad de vitoria y a parte de hablar

claro si lo que me quieren decir es que el equilibrio ecológico es el puerta a puerta pues en fin

y dígame usted si eso es el ejemplo de desarrollo ecológico con la economía con el desarrollo sostenible y con el progreso porque desde luego al partido socialista le parece

mil pasos atrás si tenemos que hablar de los debates sobre las grandes infraestructuras sobre las que hay partidos políticos que están a favor

para poner esas coletillas que empezamos a poner en todo de los lobbies y las economías y no sé que porque me parece

intentando preservar el medioambiente desde luego me parece que el gobierno vasco este el anterior y el que venga tiene la política de medioambiente

cada vez están los departamentos más involucrados que el medioambiente forme parte de cada una de las estrategias

y desde luego el de medio ambiente pero no envenenemos todos los debates haciendo creer a la sociedad que detrás de cada iniciativa que dicen algunos determinados partidos políticos

haber llegado a un acuerdo con la portavoz del partido nacionalista vasco y con el señor portavoz del partido popular y que efectivamente es imposible llegar acuerdos con un partido

en lo que es la defensa de la política medioambiental que usted señor maeztu era

pero me parece que empezamos a radicalizar un poco también temas en los que siempre había consenso y unanimidades

por lo tanto no me preocupa tanto lo de hablar en diferentes idiomas porque nos estamos esforzando en poder hablar el mismo yo por ejemplo

berak esandako hitz batzuk nahiko nituzke baita erabili berak aipatu du reconocimiento a esa larga trayectoria que entre todos llevó al nombramiento de la green capital de vitoria gasteiz eta baita

decir que votaremos a favor de la enmienda de transacción que han firmado el grupo socialista grupo popular y grupo nacionalistas vascos propuesta de transacción que nosotros compartimos y a la que en fin no veo ningún pero digno de mención por lo tanto únicamente anunciar que votaremos a favor

gracias de nuevo señora presidenta señor maeztu le voy a

contar brevemente una anécdota personal que he sufrido en mi persona cuando vitoria fue designada capital verde europea en un foro latinoamericano

a participar de él para abrirlo era una oportunidad de vender la ciudad y de vender euskadi y allí me fui

expliqué el siguiente dato en vitoria de cada cien kilos de basura que se genera solo veinticinco acaban en el vertedero lo conté porque era un dato ecológico al acabar aquella ponencia

veinticuatro millónes de habitantes me pidió una reunión

porque quería hablar de economía yo le dije he venido a hablar de ecología me dijo no de lo que ha hablado usted señor maroto es de economía porque si

pudiesemos hacer lo que ha hecho vitoria esto significa ahorrar no me acuerdo cuantos millónes de reales o de dólares o de euros

al año porque los vertederos si hacemos lo que ustedes hacen o duran cuatro veces más o hay que construir cuatro veces menos eso

como decía antes los ejemplos valen más que mil palabras que la mejor forma de luchar contra la crisis es precisamente y de evitar recortes es precisamente

políticas verdes creo que es fundamental entender esto y además creo que en esto no hay diferencias políticas igual hay diferencias personales dentro de los partidos pero desde luego

políticas quiero también decirle un par de cosas más creo que

de una ciudad como vitoria gasteiz que ha conseguido como digo ese galardón lo ha conseguido porque todos

unidad en esto el portavoz de bildu gasteiz que cree en esto introdujo en el programa oficial asuntos tan absolutamente amplios como el concepto de ecología lingüística con jornadas en defensa del euskera que yo por supuesto

ecología lingüística nuevos conceptos que se incorporan en el ámbito que estamos hablando hoy señor

el asunto el punto número dos de esa transacción dice lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a poner en valor los criterios que se valoran para la designación anual de la capital verde europea es decir aquellos

saludable y abierta a la vida criterios que valoró la comisión europea

el portavoz de bildu gasteiz porque cree en esto y defiende esto cogió un vuelo y se fue conmigo a bruselas para tener

en nombre de nuestra capital para defender juntos estos

con absoluta sinceridad si el portavoz de bildu en gasteiz cree en estos valores y se cogió un vuelo para compartir con su alcalde

iniciativas y defender la unidad política en torno a este valor si él hizo eso usted no puede hoy apretar un simple botón para que esa unidad política de la que ha gozado esta ciudad

y ese compromiso con los valores verdes de la green capital que son valores europeos así de limpios puedan seguir gozando de unanimidad en esta cámara yo creo que él que no está aquí se lo pediría yo en nombre de todos los vitorianos y

que esto debe ser una cuestión que goce de la unanimidad de toda la cámara también se lo pido creo que es una consideración absolutamente evidente más allá de las diferencias enormes entre su formación y las otras formaciones que transan este texto en materia de políticas medioambientales y infraestructuras y otros muchos en esto

la fortaleza que ha caracterizado y el objetivo que se ha perseguido es política todos hemos puesto de nuestra parte también los concejales de bildu en gasteiz yo le pido que hoy haga también eso en esta cámara y que deje estos valores a la altura de lo que han estado siempre en el ámbito de la unanimidad porque eso simplemente es una fortaleza muchas gracias

debate si gasteiz debe ser green capital o no esto no es el pleno delayuntamiento de vitoria esto es el parlamento de la comunidad autónoma vasca

y ustedes han hecho una propuesta en la que hablan de los valores del desarrollo sostenible y creo que en mi primera parte he dejado bastante claro que yo creo que hoy por hoy es totalmente contradictorio hablar

y la sostenibilidad ambiental y social por lo tanto yo me remito a estar debatiendo en un parlamento sobre las políticas que hoy en día se hacen en eso que se llama desarrollo sostenible no tengo ninguna duda que mi postura

de vitoria gasteiz sería diferente si estaríamos hablando única y exclusivamente sobre las políticas a hacer a la hora de

aunque también estoy muy convencido de lo que el portavoz

green capital y lo que piensan hoy en día de lo que al final ha sido la trayectoria de la green capital no es lo mismo y usted me ha puesto un ejemplo que es muy cierto hablar

muchas veces no se hace pero es hablar también de economía y hay que hablar también de los costes económicos que tiene no aplicar políticas

el partido popular y usted está aquí en esta cámara como representante del partido popular que es un partido que

una energía que hoy en día en el estado español

impide que energías renovables entren en la red porque se produce en continuo no se pueden desenchufar las centrales nucleares y eso entre otras cosas nos cuesta muchísimo más dinero a todos los ciudadanos y las ciudadanas y eso es la apuesta del partido popular por la nuclear por lo tanto yo no me puedo abstraer que estoy discutiendo con javier maroto sino que estoy discutiendo con el partido popular lo que entendemos

lo que es el desarrollo sostenible y cómo entendemos que debe ser ese desarrollo

y con los derechos sociales a la señora rojo simplemente que hemos tenido muchas veces aquí este tipo de debates por cierto casi siempre con posturas muy similares no sé por qué me dice que soy

de hecho le quiero recordar que yo con usted acordé la legislatura pasada

para que las explotaciones cantereras estuvieran prohibidas en los parques naturales y usted

presentó una enmienda para cambiar ese artículo quién cambio de postura señora rojo y explíqueme porqué lo hizo orduan hau ez da beharbada oso txarto

sí gracias otra vez presidenta no iba a intervenir pero como el señor maeztu me ha interpelado a mí directamente le contestaré

debatir puesto que hay una iniciativa en esta cámara pendiente de plazo de enmiendas usted sabe perfectamente por qué

una iniciativa para la modificación de esa ley y era tan fácil como que por responsabilidad yo le dije a usted en aquel debate que si su partido y todos los

están dispuestos a poner un bote común para pagar de su bolsillo del bolsillo suyo el personal no el bolsillo de la administración pública las multas y las indemnizaciones que hay que pagar a los cantereros producto de ese error

que entonces hagan lo que quieran eso fue lo que le dije y lo que le vuelvo a decir hoy porque me parece que también es de justicia que reconocer que cuando alguien se equivoca

aquello fue un error la filosofía política y el contenido político de la iniciativa presentada en el dos mil diez la sigo compartiendo hoy porque sigo creyendo

igual que sabe usted y estamos pensando la mayoría la misma cantera podemos nombrarla si queremos la cantera de mañaria la cantera de zalloventa

es que porque nos empeñemos en hacer una modificación legal en el parlamento vasco hagamos que la administración pública tenga que retraer del dinero que podría dedicarse a políticas sociales a pagar una indemnización que podemos solventar

y que ya hay sentencias pendientes de salir por las que el gobierno vasco por ese error político va a tener que pagar indemnizaciones

no quiero ser la responsable de que haya que o de subir los impuestos o de mis impuestos también

y usted sabe perfectamente que una ley autonómica no puede contradecir una ley emanada del estado porque usted lo sabe perfectamente porque es abogado usted sabe que eso no se puede hacer es ilegal y entonces está viniendo una sentencia de otra de ahí viene la modificación de esa ley

correspondiente para seguir manteniendo la filosofía inicial que era la de proteger el medio ambiente porque al partido socialista también le preocupa pero desde luego lo que no puede ser es que todos los vascos

tengamos que pagar el error político de los que nos subimos aquí pero cuando a uno le votan le votan para defender todo tipo de iniciativas pero también nos votan para ser responsables y construir país y aquello fue un error político que yo asumo

y en aquel momento el señor lópez era lehendakari y estaba gobernando y hoy es el señor urkullu pero es que

y entiendo que no me da la gana y creo que no es de recibo que los vascos paguemos errores políticos porque nos empeñemos en las tribunas en defender ilegalidades porque es una ilegalidad

en traer el mismo tema cuando usted sabe que eso es un error y sino ya le digo pongamos un bote común

y de sus bolsillos y de su dinero privado paguemos a estos lobbys económicos

y que desde luego nosotros no estamos aquí para esto pero de todas formas le diré que creo que

en nombre de mi partido y la suya tiene una gran diferencia es la diferencia de un partido político que gobierna para construir país

pancartas y paralizar todos los proyectos que nacen de donde a ustedes no les gustan pues desde luego como le he dicho antes

vascos a escote los errores políticos con el partido socialista no cuente

es el puerta a puerta pues no creo que desde luego a pueblos como pasaia le den el galardón de la green capital nada más muchas gracias

aprovecho estos minutos que me quedan para poner un pequeño contrapunto dar un recado y hacer una última consideración el contrapunto

y hemos participado en la redacción final de la enmienda de transacción pero

que se incluyen en la misma hemos tenido una pequeña discrepancia porque y esto es

esa necesidad extemporánea a nuestro modo de ver de la mención expresa a la capitalidad verde de vitoria gasteiz en las páginas webs oficiales del gobierno si cuando fue nombrada en dos mil diez el alcalde era socialista el gobierno era socialista y no fue necesario si en dos mil once en vísperas no lo

que se celebró la capitalidad verde no se pusieron los logos en las webs del gobierno y ahora en el dos mil trece una vez

como digo nos parece un poco fuera de tiempo pero bueno bien un recado al señor maroto usted ha hecho mención a que la sostenibilidad no se constriñe solamente al ámbito puramente

sino que consta de tres conceptos sostenibilidad ambiental económica social y ha mencionado la necesidad de la cohesión social estamos absolutamente de acuerdo es parte de la sostenibilidad y le quiero transmitir

que dicen que tuvieron que hacer verdaderos esfuerzos para incluir en la programación de la green capital un paquete desde una perspectiva más social y que por mucho que haya terminado oficialmente la capitalidad verde europea con el año dos mil doce

una ciudad sostenible hay que atender con más cariño

sin que sea necesario el que otras fuerzas políticas mejoren la propuesta inicial y para terminar ba eh bilduri

oso laburra izango naiz eta eskainutik zure baimenarekin egingo dut hemos alcanzado un acuerdo los grupos enmendantes y el grupo proponente en torno a una cuestión que yo creo que es de todos conocida en esta cámara al final todos funcionamos con el reglamento de la cámara y lo que solicitamos es algo muy simple y muy sencillo

en el plazo de un mes se constituya la ponencia en el seno de la comisión del reglamento con dos objetivos fundamentales que además yo creo que fue

en torno a la mejora del funcionamiento de la cámara y por lo tanto a la modificación sustancial que se hizo en el reglamento que era

permanente y eso es lo que se solicita con esta iniciativa hoy aquí que se constituya la ponencia uno para que se haga un informe de evaluación del reglamento a fecha

encima de la mesa en esa ponencia a debate todas aquellas cuestiones que por parte de los grupos consideremos que pueden ser de interés para mejorar la vida en la cámara

en mi iniciativa otros grupos no han presentado

y por nuestra parte nada más agradecer el acuerdo a los grupos que han suscrito el acuerdo transaccional con nosotros y esperamos el apoyo del resto de los grupos de la cámara nada más y muchas gracias

taldearen ordezkaria quiroga andrea zurea da hitza gracias señora presidenta y desde el escaño si me permite simplemente para

felicitarnos por el acuerdo logrado efectivamente el grupo popular había presentado enmienda porque consideramos que el reglamento debe ser un instrumento vivo capaz de adaptarse a las nuevas necesidades que se van planteando en el día a día de la vida de la cámara yo creo que podemos agilizar algunos

de los trámites y de las iniciativas que se van desarrollando en la cámara todos seguramente estamos viendo cosas que se podrían mejorar y lo deseable es

su modificación por tanto simplemente congratularnos como decía del acuerdo y esperar que se cumpla ese número dos esa segunda parte y que

se constituya esa comisión para que se pueda empezar a trabajar nada más muchas gracia eskerrik asko

efectivamente estábamos de acuerdo no teníamos ningún problema con votar a favor de la iniciativa original

ciertamente razonables y sensatas las dos enmiendas presentadas por el grupo popular y por el grupo nacionalistas vascos

el grupo socialista en concreto proponía tres objetivos concretos que nosotros compartimos y nosotros estábamos dispuestos a favor de votar a favor de esa iniciativa

que lo más sensato sea que se ponga en marcha esa ponencia que se ponga en marcha cuanto antes y ya en esa ponencia cada uno de los grupos plantee todo aquello que considere necesario para conseguir el objetivo final de mejorar el reglamento en lo posible